autoridad vasca de la competencia delakoak eusko jaurlaritzaren menpe dagoen erakundeak gipuzkoako

gracias presidenta buenas tardes de manera muy breve para explicar que upyd ha presentado no

enmienda de totalidad que es idéntica a la presentada por el grupo nacionalistas vascos y que es muy semejante a la presentada por el grupo socialista es

el punto cuatro de la enmienda de transacción debatida y aprobada en la diputación permanente del día dieciocho de julio de este mismo año

apoyamos en aquel debate por lo tanto es la misma enmienda que hemos presentado hoy concretamente uno de los puntos de esa enmienda de transacción

el día dieciocho de julio lo cierto es que la iniciativa planteada por eh bildu no es que proponga algo valiente como la portavoz del grupo ha planteado sino que propone algo directamente ilegal y por lo tanto nuestra obligación como representantes de los ciudadanos es rechazar esa iniciativa planteada por eh bildu y defender la nuestra lo que proponemos concretamente en esa enmienda de transacción que hemos firmado es que este parlamento inste al gobierno vasco a que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos que vaya a licitar

estén reguladas en base a un convenio colectivo digamos que esta enmienda de transacción que es la misma enmienda de totalidad que ha presentado upyd

la oposición de upyd a las medidas más claramente restrictivas de la última reforma laboral y nuestro compromiso y voluntad política de superar la inseguridad jurídica

desde la infausta última reforma laboral una reforma laboral que hemos criticado de manera contundente y de manera reiterada porque es claramente injusta lamina derechos laborales y no crea empleo sino que directamente

ante la duda de la legalidad que este tipo de cláusulas

ante la duda de la legalidad que pudiera plantear algún grupo nosotros consideramos que sería

que se realizara una consulta a la junta asesora de contratación administrativa del país vasco o a la junta consultiva de contratación pública órganos consultivos recogidos

expresamente señalados en los artículos trescientos veinticuatro y trescientos veinticinco de dicha ley en todo caso creo que es una enmienda de transacción que puede ser apoyada por una mayoría de grupos me parece que es razonable y por otro lado yo digo que es la misma enmienda

que ya se debatió y ya se votó y ya se aprobó en este parlamento hace apenas cuatro meses gracias eskerrik asko

gracias presidenta buenas tardes señorías señora zulaika compartiendo buena parte de la intervención que usted ha hecho

con unión progreso y democracia y también con el partido nacionalista porque coincidentemente nuestras enmiendas de totalidad son idénticas

están entresacadas del acuerdo que se tomó en la diputación permanente del dieciocho de julio

digamos de calaje o no sé cómo decirlo porque aquí los temas no van por orden de aparición como en los créditos de las películas sino que ustedes presentaron

concretamente el nueve de julio el plazo de finalización de enmiendas fue el diez de septiembre entre tanto ocurrió ese acuerdo de la diputación permanente pero luego más adelante presentaron una moción consecuencia de interpelación el ocho de octubre

de los convenios laborales en obras públicas y de aquella iniciativa si recuerda usted salió adelante una enmienda que presentaba el partido socialista

del texto refundido de la ley de contratos del sector público apruebe un pliego de cláusulas administrativas generales en el que se contenga una cláusula que exija el sometimiento a los convenios territoriales de todo adjudicatario o subcontratista de cualquier tipo de obra o servicio que se licite en el sector público vasco y que sancionen el incumplimiento de dicha cláusula

más allá de cuestiones competenciales en materia de legislación nosotros sí tenemos en materia de desarrollo legislativo por eso hacíamos esta propuesta

porque hay una habilitación que le da la ley de contratos del sector público al gobierno vasco para que redacte

a que haya un sometimiento expreso a los convenios territoriales esto por supuesto favorece a los trabajadores locales y a los foráneos pero también quiero decir que favorece a las empresas locales

las empresas locales están obligadas a cumplir con los convenios de aplicación

que no se someten a esos convenios normalmente con peores condiciones y si los tienen y que pudieran por eso encontrar mejores condiciones para la licitación y para los precios de remate por lo tanto entendemos que ese acuerdo no daña la competencia al contrario la mantiene en los niveles de competencia razonables

en que cuando se hacen pliegos de condiciones siempre a la hora de

unitarios si se trata de obras se tienen en cuenta los costes laborales del lugar por esa razón entendemos que ese acuerdo que se adoptó entonces el diecisiete de octubre

cobre carta de naturaleza mediante un pliego de cláusulas generales que como digo

y por lo tanto contienen declaraciones jurídicas económicas y administrativas que son de aplicación en principio a todos los contratos de un objeto análogo además de lo establecido en la legislación de contratos de las administraciones públicas creemos que ese acuerdo

refuerza la posición que ustedes traen le da carta de naturaleza mandata al gobierno a llevar a cabo una acción concreta que

y subsumir en ellos esta cuestión de sometimiento a los convenios territoriales

de sanción de resolución de los contratos eso es lo que pretendíamos eso es el tenor literal y entendemos que de esa manera

el bien jurídico que ustedes plantean que son los derechos de los trabajadores de aquellas empresas que contratan

en el ámbito vasco claro nosotros hemos tenido que hacer la transacción porque dado que la enmienda coincidente con estos otros grupos era idéntica y se basaba en ese acuerdo del dieciocho de julio por una razón de pura coherencia y por las fechas en la que se redacta no íbamos a apartarnos de ese dicterio establecido en aquel momento

no supone apearse de ningún aspecto simplemente es coherente y concordante

pero entendemos que ese acuerdo del diecisiete de octubre que es más reciente tiene suficiente fuerza para que en el caso de que el gobierno decida cumplir con ese mandato parlamentario esperamos que en el tiempo de más en el que se le insta pues que tenga esa fuerza obligacional para toda la contratación de todo el sector público vasco

aquella resolución es una resolución que protegerá de mejor modo

batera no votaremos a favor de la iniciativa de

como saben nosotros no tenemos competencias legislativas en el ámbito de contratación pública únicamente tenemos

en aquellos extremos que no estén declarados como legislación básica y también saben que el texto refundido de la ley de contratos del sector público es

o interrumpir los contratos que están en vigor supone una exclusión discriminatoria no permitida por la ley y establece de hecho una prohibición de contratar

en la ley de contratos del sector público las causas de prohibición como todos ustedes saben están tasadas en la ley concretamente en el artículo sesenta y esas prohibiciones nos obligan por lo tanto puede un pliego de condiciones administrativas particulares o generales señor itxaso establecer provisiones distintas a las previstas en la ley la respuesta es que no las prohibiciones solo pueden ser establecidas en la ley

lo ha venido confirmando el tribunal supremo al afirmar que no es dudoso que la capacidad para contratar y todo lo que sobre ella incide

constituyen materia reservada a la ley establecida a la conclusión anterior que es premisa de nuestro razonamiento y relacionándola con la cualidad de la norma impugnada es patente la nulidad de esta

mediante normas que tengan rango inferior a la ley y mucho más si tienen tan ínfima jerarquía normativa como la que corresponde a la que

los pliegos de condiciones particulares aprobado por orden de la consejería las autoridades administrativas carecen de facultad para incorporar prohibiciones contractuales a los contratos que celebren por muy razonables que estas prohibiciones puedan parecer en conclusión ante la ilegalidad

hemos optado por presentar como ya se ha mencionado el acuerdo al que alcanzamos en la diputación permanente

nos guiamos por el principio de seguridad jurídica y desde luego que no es nuestra intención

en nuestros pliegos de cláusulas que nos puedan llevar a tener la contratación administrativa judicializada y ya le adelanto

tenemos todas las de perder el tema por lo tanto está claro no se puede excluir a una empresa de una licitación por el hecho de estar cumpliendo con la ley

que la ley nos puede gustar más o menos o no gustarnos nada como es en este caso pero lo que es evidente es que no se puede conculcar el derecho de una empresa

por qué y porque esté cumpliendo con la ley eskerrak eman nahi dizkiet itxaso jaunari

en realidad yo voy a ser bastante breve porque este debate es antiguo

en el concepto inicial no tanto

o plantear que se incumplan las leyes eso es bastante nuevo en este parlamento pero no lo es

lo que estaba ocurriendo en diversas obras públicas que con dinero público de las administraciones vascas

o en los vascos sino que se generaba empleo en otras empresas que contrataban a trabajadores de fuera eso sí

como los portugueses que claramente discriminaban

y eso ha seguido ocurriendo pese a que en este parlamento se tomó una iniciativa yo creo que prácticamente por unanimidad

y a las administraciones vascas que modificaran las condiciones de las cláusulas de los contratos para exigir que se cumplan los convenios provinciales

y que por lo visto no lo hemos conseguido en la legislatura pasada tampoco esta pero aprovechando que la reforma laboral pasaba por aquí

aunque no existiera la reforma laboral cuando pasaban estas cosas entonces a la propuesta de bildu de que se incumpla la ley

evidentemente no podemos votar a favor ni siquiera abstenernos

incumplir las leyes si ustedes lo consideran conveniente si creen que es lo que hay que hacer

que ustedes luego no incumplen y a los demás grupos

a que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos que vaya a licitar

como lo están todas las portuguesas por poner un ejemplo y que ya lo dijimos

por recordarlo y teniendo en cuenta que tenemos unos sindicatos principalmente nacionalistas opuestos a que las empresas vascas tengan convenios colectivos pues uno se pregunta si en este parlamento se trata de favorecer

que son las que mayoritariamente tienen convenios colectivos

o tengo que recordarles a ustedes que son precisamente las empresas vascas

fantástica actuación en defensa de los trabajadores de los sindicatos nacionalistas y ahora nos proponen

y a esos trabajadores porque son mejores otras empresas que sí tienen convenios colectivos yo la verdad

sigo sin entenderlo pero bueno ustedes sabrán

nos dice que está prohibido poner condiciones y prohibiciones a la contratación porque la ley dice lo que dice

inventarse requisitos que la ley no plantea no es lo mismo o como lo ponemos en forma positiva eso sí es legal

decís que no es legal lo que proponemos de qué ilegalidad estamos hablando

para consagrar la prioridad de pago de la brutal deuda o como vemos los últimos días de la legalidad de los demócratas del partido popular que van a impedir

de esa legalidad estamos hablando menos hipocresía y más valentía distingamos de una vez entre legalidad y justicia y empecemos a hacer leyes

con y para las mayorías sociales que es lo que continuamente nos están demandando y en este sentido este es el sentir que proponemos con esta propuesta

lan erreformaren ondorioz y respecto a esa valoración positiva que se propone me pueden asegurar ustedes que algo va a cambiar mañana

están reivindicando un convenio propio ante la rebaja unilateral de sus condiciones laborales

más de un veinticinco por ciento de rebaja salarial por la aplicación del convenio estatal o la clínica álava u otras tantas

sí es posible que este debate sea antiguo no sé cuánto de antiguo pero

no hayan servido para resolver las cuestiones y a día de hoy la cuestión que plantea el grupo eh bildu sigue siendo una cuestión

a día de hoy tiene usted razón el acuerdo de hoy no resuelve las cosas por eso en mi primera intervención le he explicado

de las fechas la interrupción por parte de las mociones que plantean otras cuestiones y que dan lugar al mismo debate pero surge entonces aquel acuerdo del que le he hablado

un buen blindaje porque como decía el artículo sesenta y seis del reglamento plantea que esos pliegos contienen las declaraciones económicas administrativas y jurídicas y esto

estamos convencidos de que eso tiene salida y además tiene razón en que no será suficiente nosotros hablamos de los convenios territoriales del lugar donde se hacen las obras no de cualquier convenio porque aquí habrá que tengan un convenio efectivamente puede ser un convenio

que tenemos en los territorios los que hay que proteger y defender por eso es verdad tiene usted razón pero por esa razón que ya le he explicado reiteradamente vamos a votar nuestra enmienda de transacción sin que eso excluya
compartir en buena medida su intervención nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso

porque ustedes no han planteado hoy que se modifique esa legalidad no han traído aquí la propuesta

ni aquí ni donde podrían hacerlo porque lo podrían hacer que es en el congreso de los diputados en este caso tampoco lo han hecho ustedes han traído aquí una propuesta que dice que no se cumpla la ley bueno que el gobierno vasco no cumpla la ley desde luego ustedes eso no lo aplican en la diputación de gipuzkoa o sí

y en el ayuntamiento de san sebastián a qué hemos venido

vienen ustedes a decirle al gobierno vasco que incumpla la ley que ustedes por lo visto cumplen a pies juntillas y que no nos lleva a ningún lado

porque claro que se nos diga desde el partido nacionalista vasco claro que es ilegal

y lo que ustedes plantean porque nosotros hace tiempo la legislatura pasada planteamos que se ponga condición que se apliquen los convenios provinciales

y aquí no lo ha aplicado nadie y aquí estábamos todos de acuerdo en eso y por qué no lo han aplicado entonces

y segundo si es tan malo no tener convenios colectivos en las empresas señores nacionalistas de uno y otro sitio por qué no hablan con los sindicatos afines y homónimos y les instan a que las empresas vascas tengan convenios colectivos y

a los concursos de las administraciones públicas porque según ustedes no deberían de poder hacerlo a qué estamos jugando

a poner el requisito de que tienen que saber euskara todos los de la empresa

muchas gracias presidenta para demostrar lo relativo de la legislación vigente traemos una iniciativa que tiene que ver con una directiva europea que pondrá
antes que después en orden la legislación española en materia hipotecaria

la ley hipotecaria que es de mil novecientos cuarenta y seis hay otra ley que es

sobre regulación del mercado hipotecario la ley cuarenta y uno barra dos mil siete que modifica la anterior flexibilizando la movilidad de clientes entre los distintos prestamos la propia ley de enjuiciamiento civil

no hace tanto artículo seiscientos ochenta y cinco y siguientes por qué traemos esta iniciativa

la crisis económica así llamada ha traído como consecuencia que entre el año dos mil ocho y dos mil doce los desahucios bueno también se llama lanzamientos que ya tiene solo el nombre una resonancia medieval y feudal por eso hablaremos de desahucios que han aumentado de forma dramática

ha sido consecuencia en fin de toda una serie de prácticas que han dado lugar finalmente también a una reconfiguración del mapa bancario fusiones nacionalizaciones rescates por cierto hablando de rescates creo que se cifraba ayer escuchaba en cincuenta y tres mil doscientos millónes el rescate de la banca de los cuales se considera que treinta y siete mil son irrecuperables

muy difícil de cuantificar los datos no son del todo precisos hay diferentes fuentes por ejemplo los notarios hablan de que entre el dos mil siete

locales sin embargo la plataforma antidesahucios habla de que en ese periodo

es verdad que izquierda unida a través de su portavoz el señor callo lara hizo una pregunta al gobierno y

subiendo y que las ejecuciones sin tramitar ascenderían a finales de dos mil doce a un total de ciento noventa y ocho mil ciento diecisiete este primer trimestre de dos mil trece casi veinte mil se han producido como digo consecuencia de la burbuja inmobiliaria

entre bancos favorecía que estos dieran no el cien por ciento sino mucho más y entonces todo esto se ha convertido al final en activos tóxicos como

y sabemos que están ahora en manos del banco malo que lejos de favorecer o de mejorar la situación la está empeorando en materia de desahucios en concreto luego hablaré de ello amnistía internacional en un informe de dos mil trece

varios casos de desalojos forzosos en cañada real en puerta de hierro termina diciendo si

que el derecho a la vivienda no se encuentra protegido en españa existe en la constitución pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el tribunal constitucional hombre

del país y de una constitución que en cambio lo consagra luego hubo más adelante también un dictamen de la abogada general del tribunal de justicia europeo la señora juliana kokott que considera en dicho dictamen

en la que se regula las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y que la legislación española lo vulnera directamente dicho informe se basa en una demanda que puso el ciudadano mohamed aziz

y esto dio lugar después a una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea el catorce de marzo que dictaminó que las leyes españolas sobre desahucios no garantizaban a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera por tanto la normativa comunitaria en concreto la citada directiva

que la ejecución hipotecaria tendría que ser el último recurso desde mil novecientos setenta y ocho se viene cuestionando los procedimientos de ejecución forzosa

y desde entonces pues se le da vueltas a esto pero solo ha sido en este último periodo comprendido en este tramo de crisis cuando

los informativos se llenaban de noticias trágicas cuando se ha empezada o poner un poco de interés y ha habido una tibia

en el ámbito del estado español pero afortunadamente como decía al principio para superar este relativismo de la leyes viene una directiva europea que va a imponer la obligación de transponerla esa directiva europea que todavía no está aprobada del todo

si se quiere en una iniciativa preventiva o apremiante pero pretendemos efectivamente

inmediatamente a diferencia de lo que nos pide la enmendante señora llanos que dice que lo más breve posible nosotros décimos que inmediatamente es más

social y de derecho tendría que empezar hacerlo ya porque no es necesario esperar ni a la aprobación de la directiva

adoptan algunas de las disposiciones contenidas en esta directiva

es un poco farragoso pero me veo en la obligación de tener que diseccionar aunque sea brevemente

entonces el artículo uno declara que la directiva se refiere al crédito hipotecario otorgado al consumidor va referido

de hipotecas el artículo dos fija el ámbito de aplicación de la directiva que comprende

justamente lo que acabo de decir que no impide que los estados puedan incluir otros supuestos

un rosario de términos el artículo cuatro exige a los estados miembros que designen autoridades

es decir órganos que van a controlar efectivamente el cumplimiento de esa directiva el artículo cinco normas de conducta en la concesión de crédito a los consumidores y el seis

como por ejemplo la obligación de actuar en el mejor interés del consumidor los requisitos en el sentido de poseer un nivel adecuado de conocimientos y competencia es decir explicar a la gente y sobre todo asegurarse de que han comprendido y han entendido los términos del contrato cosa que no siempre ha sucedido el artículo siete

introducen principios generales aplicables a la comunicación publicitaria y comercia en definitiva lo de la publicidad engañosa

el artículo nueve establece la obligación de que los prestamistas y los intermediarios de crédito ofrezcan en todo momento información general sobre la gama de productos de crédito disponible es decir

llevar al huerto al solicitante el artículo diez

información sobre su identidad situación legal y vínculo con el prestamista importante también el artículo once explicaciones adecuadas introduce la obligación de que la fase precontractual

de crédito ofrecido que se corresponderán con el nivel de conocimientos y experiencia del consumidor en materia de crédito es decir no venderles una cosa que no está

asociada a la naturaleza del solicitante el artículo doce cálculo de la tasa anual equivalente también muy importante porque con esto se suele hacer

en caso de variar el tipo deudor es decir cuando cambian los tipos también

el artículo catorce evaluar la solvencia del consumidor hemos visto que a veces se han dado créditos como en una tómbola evaluar realmente si esa persona va a poder

el artículo quince establece la exigencia de una contratación de prestamos responsables es decir que el prestatario facilite también pedirle al prestatario mucha información

accesos a la bases de datos introduce disposiciones dirigidas a garantizar

obtener información de las bases de datos de forma no discriminatoria normas de asesoramiento en el artículo diecisiete artículo dieciocho reembolso anticipado

anticipadamente lo que se llama cancelación por desistimiento los artículos diecinueve a veintidós

supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos tanto de acceso al ejercicio de la actividad pues en fin un mayor control de los operadores el artículo veintitrés estipula que las entidades deben estar sujetas a una autorización una inscripción y un registro y una supervisión adecuada ya era hora también de que todo esto tenga una supervisión efectiva

todo esto se va a disciplinar algo el artículo veinticinco establece la obligación de que los estados miembros designen organismos de reclamación extrajudiciales para resolución de litigios entre prestamistas y consumidores

puedan ser adaptados a cada realidad nacional el artículo veintinueve de carácter obligatorio y el artículo treinta estipulan respectivamente que los estados miembros deben trasponer la directiva y cómo ha de efectuarse es decir esto es muy importante porque a veces en las operaciones de transposición suele haber a veces

aquí va a haber una supervisión para que la transposición sea leal y fiel al espíritu que anima la directiva

nada despreciable que es la posibilidad de un reexamen a los cinco años las autoridades europeas reexaminarán si esta directiva y sus transposiciones

respuesta a la cuestión planteada y a los temas que trata de resolver por lo tanto ese mecanismo de reexamen será también una buena noticia si los poderes públicos no aplican debidamente el espíritu de esta directiva o no la transponen debidamente cosa que no parece probable si va haber esa supervisión

que parecen un poco farragosas es por lo que yo les pido a ustedes su apoyo a nuestra iniciativa al objeto de que efectivamente el gobierno de españa tan pronto como le sea posible probablemente no antes de que se apruebe la directiva aunque como digo

en el momento en que tengan ese mandato de la unión europea pues no les quedará otra y por lo tanto

los dramas que supone y la inseguridad con la que se han encontrado muchos solicitantes y personas que tienen un crédito hipotecario por todo esto es por lo que

nada más y muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta buenas tardes a todos se decía antes que se debatía un tema

pues aquí este es otro de estos temas que ya en varias ocasiones lo hemos debatido en esta cámara de hecho la semana pasada estábamos debatiendo otro aspecto

a este grupo no le importa debatir cuantas veces sea necesaria porque evidentemente la protección

para todos los aquí presentes y desde luego también para el grupo popular ha presentado el señor itxaso y tal y como ha sido la presentación parece

tan exhaustiva que parece que aquí se tuviese que votar la directiva

la directiva europea sobre prestamos hipotecarios desde este grupo parlamentario como no puede ser de otra manera damos la bienvenida

porque allí donde se presenten medidas que a nuestro juicio puedan reforzar

nos podremos encontrar todos estamos de acuerdo que miles de personas y de familias están sufriendo un calvario con la pérdida de su vivienda la crisis económica que algunos le han llamado así ustedes eran los que no querían llamarla así señor itxaso
que era una crisis económica en toda regla isiltasuna mesedez

se ven imposibilitadas a la hora de afrontar el pago de sus cuotas hipotecarias somos conscientes nosotros los primeros de que esta situación se ha convertido en un verdadero drama social y que entre todos

pero debemos de hacerlo alejándonos de tentaciones demagógicas que en muchos casos esconden intereses malintencionados señor itxaso una vez más tengo que destacar en esta tribuna las prisas y las urgencias

en la oposición parece que los desahucios nacieron ayer

para que se haga una normativa y dónde estaban ustedes para modificar esa normativa porqué no lo hicieron antes se lo dije en la anterior sesión plenaria es una lástima sobre todo para el conjunto de la ciudadanía que esas urgencias y esa profusión de soluciones para los ciudadanos se les ocurran siempre cuando traspasan la puerta de salida de sus responsabilidades de gobierno y lamentamos que ustedes se inspiren y se iluminen cuando se instalan en la oposición porque si les hubiera llegado la luz con mayor premura cuando estaban en el gobierno con toda seguridad los ciudadanos se hubiesen ahorrado muchísimos problemas y muchísimos desahucios la proposición hace una crítica a la legislación nacional en esta materia y la califica de incompleta

a la futura normativa europea pero desde una postura seria y reflexiva que no solamente la dice el grupo popular sino que la dicen también numeroso expertos

explicaré porque por mucho que usted diga ha sido el gobierno del partido popular el que ha intentado legislar nada más entrar en el gobierno

de los desahucios mientras que otros gobiernos aquí y en madrid miraban hacia otro lado en primer lugar aprobaron el código de buenas prácticas

en que las personas sin recurso pudieran proceder a la reestructuración de la deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad de sus obligaciones

ese plan de reestructuración pretende establecer un mecanismo de flexibilidad

a las obligaciones hipotecarias con el objeto de evitar un proceso

se podrá solicitar una quita de la de deuda en un veinticinco por ciento y en caso de que esta fórmula no sea suficiente

a la dación en pago que supondrá la cancelación total de las obligaciones contraídas se suspenden además los lanzamientos por un periodo de dos años se limitan los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero se establecen medidas que garanticen la independencia de las sociedades de tasación con el objeto de que estas no actúen al servicio de las entidades de crédito y que no haya conflicto de intereses y así mismo

y se eleva el precio de adjudicación del bien hipotecado del

legislar se ha legislado cosa que antes no se hizo se pretende ofrecer una respuesta a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad para algunos ya comprendemos que nada es suficiente aunque nada hubieran hecho cuando podían hacerlo y siempre

proponen medidas que ni la propia normativa europea a la que tanto alaban porque impulsan allí lo que aquí se oponen a hacer

por el gobierno de españa simplemente lo que le solicitamos señor itxaso es que abandonen discursos instalados en posiciones populistas y demagógicas que tienen una inviabilidad manifiesta

como por ejemplo ambas están dirigidas a aumentar la protección de los consumidores la norma europea como usted ha dicho establece un periodo de reflexión anterior y posterior a la firma de la hipoteca de siete días la normativa nacional exige

de los riesgos que conlleva su contrato a ello hay que sumar que el notario podrá detener la firma de la hipoteca si se detectan cláusulas abusivas

establece garantías para evitar la concesión de prestamos irresponsables la legislación aprobada por el gobierno de españa

las recomendaciones de la comisión europea una limitación a la concesión del crédito hipotecario de un ochenta por ciento del valor de tasación y una duración máxima de treinta años para evitar

con esta medida se ha pretendido poner fin a una política crediticia expansiva

la denuncia no fue atendida perseguía poner fin a esa práctica generalizada de conceder prestamos por un importe del ciento veinte por ciento del valor de inmueble y por un periodo de hasta cuarenta años

la nueva directiva expresa que la legislación no se podrá oponer a la dación en pago si previamente las partes la han pactado es decir

ni con carácter retroactivo y en torno a este asunto la normativa nacional también contempla la posibilidad de que la dación en pago

posibilidad está incluida en el artículo ciento cuarenta de la ley hipotecaria

en la escritura de constitución de hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados y la nueva

obliga a las entidades de crédito a tener que aceptarlas y los colectivos más vulnerables acreditan

por tanto con todo esto se puede concluir que la normativa europea y la nacional comparten

en muchos aspectos mayores garantías para los deudores hipotecarios y esto señor itxaso lo que pone muy a las claras es el doble rasero y la doble vara de medir de los diferentes grupos políticos aquí presentes que aplaudieron

porque como decía la normativa comunitaria ha sido aprobada por la totalidad de los grupos políticos con representación en esta cámara a través de los respectivos grupos parlamentarios es decir

y no solamente votan en contra lo que apoyan luego en europa sino que además

contra un gobierno que se anticipó y legisló a lo que ahora proponen

y esto pone muy a las claras señor itxaso cuál ha sido el objetivo encabezado por el partido socialista y el resto de formaciones entorno a los desahucios que es

es legítimo incluso considerarla insuficiente pero lo que no es admisible señor itxaso es que usted hoy venga aquí a alabar una normativa

que se han opuesto en el congreso de los diputados y quizás la doble moral que algunos practican reside que en europa sí hacen planteamientos políticos serios rigurosos y posibilistas y en cambio en otros foros no no es omisible que durante la tramitación de la legislación sobre la protección de los deudores hipotecarios

se respaldaran escraches contra políticos del partido popular exigiendo la dación en pago universal y retroactiva y por el contrario en europa este tipo de reclamaciones

nuestro grupo entiende que una máxima de la política debe de ser predicar con el ejemplo y es evidente que determinadas formaciones no lo llevan a cabo el gobierno

de pisos sociales por impago de cuotas hipotecarias

dos formas de gestión mientras que la comunidad de madrid ha puesto a disposición de las personas afectadas por desahucios

termino expresando que nosotros apoyamos la normativa europea y aceptamos de buen grado que todos aquellos aspectos de la misma

se incorporen cuanto antes porque el grupo popular estará en cualquier iniciativa que pueda evitar el drama de los desahucios pero lo hará siempre desde la responsabilidad la seriedad y el rigor legislativo

muchas gracias buenas tardes de nuevo debatimos

una directiva ya aprobada al menos parcialmente en el parlamento europeo y cuyo contenido no ha querido ser impulsado en el congreso de los diputados ni por parte del partido político que presenta

es decir el partido socialista obrero español ni tampoco por parte del único grupo que ha enmendado esta iniciativa es decir el partido popular es ciertamente curioso por qué el partido popular

propuso todo esto que aquí ahora se defiende y que ha sido parcialmente aprobado en el parlamento europeo por qué todo esto no se propuso en el congreso de los diputados y sin embargo cuando ya han salido del gobierno lo plantean no ya en el congreso de los diputados sino en el parlamento vasco cuando no tenemos ni siquiera competencias es ciertamente curioso y digamos que dibuja un escenario ciertamente desolador

durante los últimos años y en españa durante los últimos años no ha gobernado upyd

y después ha gobernado el partido popular y todas estas iniciativas que ahora se defienden o muchas de ellas no han sido defendidas no han sido aplicadas

esas leyes injustas no se quisieron modificar nosotros

ya votamos a favor de la creación de un marco de crédito hipotecario en toda la unión europea y destacamos el trabajo decisivo del parlamento europeo y décimos y decíamos en aquel debate que gracias a la normativa europea

los ciudadanos gozarán de una mayor protección cuando suscriban una hipoteca sin que esto quiera decir como ya se ha dicho que esta normativa

nosotros a través de nuestro eurodiputado ya valoramos positivamente muchas de las novedades incluidas en esta normativa entre otras el periodo obligatorio de reflexión para el consumidor el registro y supervisión de las entidades vendedoras de hipotecas y la introducción de la posibilidad de la dación en pago como medida resolutiva de un contrato

la nueva normativa europea ya se ha dicho pretende remediar las deficiencias

a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca así como a los contratos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios

reglas se adaptarán a los distintos mercados hipotecarios de los estados miembros pero la información al consumidor tendrá que presentarse en un formato homogéneo en toda la unión europea la directiva prohíbe la publicidad engañosa y exige una información más clara acerca de las condiciones y riesgos de los contratos contraídos el consumidor dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario

según lo decida cada país antes de firmar cualquier contrato el consumidor tendrá que recibir

información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito para conocer el coste actual y las consecuencias financieras

y en relación a los desahucios la directiva exigirá una

es lo que dice expresamente esta directiva una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones limitara los cargos por impago e impedirá a los estados miembros

entre las partes así mismo se exigirá a los países de la unión europea que adopten fórmulas para buscar el mejor precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones protegiendo a los consumidores y evitando el sobreendeudamiento

por su parte los consumidores estarán obligados a detallar su situación financiera y los prestamistas deberán

a aquellos prestatarios que no se ajusten a las condiciones establecidas con ello se pretende frenar la concesión de hipotecas a personas que no puedan pagarlas ya se ha dicho la legislación introduce una mayor flexibilidad para amortizar la deuda como por ejemplo el derecho del prestatario para pagar el prestamo antes de tiempo la entidad bancaria tendrá por su parte el derecho a recibir una compensación justa

pero no podrá imponer multas adicionales para desincentivar esa amortización y otras cosas más que ya ha enumerado el señor itxaso aprobada la directiva en parlamento europeo queda ahora pendiente que este y el consejo acuerden cómo supervisar la transposición de estas normas por los estados miembros

los estados miembros tendrían un plazo de dos años para adaptarla a sus legislaciones nacionales una directiva por lo tanto positiva

en contra de lo que en ocasiones pudiera parecer especialmente en los últimos tiempos vienen también cosas positivas

la iniciativa del grupo socialista en la que propone que este parlamento valore muy positivamente el proyecto de primera directiva europea destinada a regular los prestamos hipotecarios y pretende que instemos así lo aremos al gobierno de españa que una vez aprobada definitivamente proceda a su inmediata

hipotecaria española y en ese sentido propone que instemos a una serie de modificaciones legales que nosotros podemos compartir modificación de la ley hipotecaria de la ley de enjuiciamiento civil de la ley de regulación del mercado hipotecario

y de la ley de subrogación y modificación de prestamos hipotecarios procediendo a una homologación de la legislación estatal con la europea las posibilidades de la dación en pago nosotros ya propusimos esto en el congreso de los diputados y votaron en contra propusimos esto mismo

con poco éxito que restrinja los intereses de demora nosotros ya propusimos esto en el congreso de los diputados en esta legislatura y en la anterior y ustedes votaron en contra y que prevenga el sobre endeudamiento nosotros ya propusimos esto

en esta legislatura y en la anterior y no fue posible sacarlo adelante en conclusión votamos de propuestas algunas de las cuales nosotros hemos venido defendiendo contra viento y marea contra el criterio durante demasiados años

es decir el partido popular y el partido socialista obrero español esperamos que cuanto antes estas reformas se lleven a cabo estas

que pudieron aprobarse antes durante los últimos años y que desgraciadamente como consecuencia de que no hubo una voluntad política no pudieron aprobarse

todo esto o al menos parte de esto o incluso esto y algunas otras cosas no se llevaron a cabo antes por qué

no se llevaron a cabo antes en el congreso de los diputados hubo tiempo y hubo grupos políticos minoritarios sí que lo pusieron encima de la mesa encima del debate una y otra vez y no fue posible

algún cambio ha podido haber en todo caso insuficiente

pero el drama social no cae del cielo

social se produce como consecuencia de que existen situaciones injustas

injustas como consecuencia de leyes injustas que el partido socialista especialmente durante largos años y el partido popular también no quisieron modificar

no viene porque sí la crisis económica no viene por que sí

como consecuencia de gobiernos de españa que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento y como consecuencia de eso el drama social los desahucios la pobreza el incremento de la desigualdad el incremento del paro

por lo tanto el drama social no cae del cielo es consecuencia de decisiones equivocadas y de decisiones no tomadas a pesar de que hubo grupos políticos

las modificaciones de leyes injustas por no hablar de la quiebra

o de la estafa de bankia por no hablar de la estafa de bankia o de la quiebra de las cajas de ahorros consecuencia de la politización de las cajas de ahorros

y la quiebra de bankia no viene como consecuencia de la nada

es consecuencia directa de una politización de las cajas de ahorros auspiciada y mantenida en el tiempo durante largos años por el partido popular y por el partido socialista en definitiva efectivamente cuando hay leyes injustas lo que hace falta es voluntad para llevar a cabo esas modificaciones necesarias no se quiso hacer no hubo voluntad política para hacerlo había mayorías

nos parece bien que se proponga que se haga pero se tenía que haber hecho mucho antes

de otra manera nosotros votaremos a favor de la iniciativa del grupo socialista eskerrik asko maneiro jauna

berehala egitea estamos a favor de la inmediata transposición de la directiva europea

y por la que se modifica la directiva dos mil ocho barra cuarenta y ocho la síntesis de esta directiva viene recogida en su considerando sexto donde dice que la presente directiva

interior más transparente eficiente y competitivo mediante unos contratos de crédito coherentes flexibles y equitativos en materia de bienes inmuebles

y la contratación de prestamos así como la inclusión financiera y proporcionando por tanto un nivel elevado de protección a los consumidores

donde el objetivo de esta presente directiva consiste en garantizar que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito para bienes inmuebles disfruten de un elevado grado de protección

los procedimientos de ejecución forzosa se vienen cuestionando desde mil novecientos setenta y ocho por lo menos que se puede cuestionar algo

y claro lógicamente eso quiere decir que los gobiernos han tenido responsabilidad y tienen

incluso me atrevo a decir que si a veces los gobernantes

poderes financieros por eso elogiaba la directiva porque su transposición obligada

no tengan la importancia o el efecto que igual hasta ahora han tenido entonces no tengo ningún problema en realizar la autocrítica que corresponda efectivamente responsabilidades las hay de mayor o menos grado pero las hay efectivamente en este estado de cosas cuando nosotros traemos esto aquí es para superar el estado de cosas y como dice la señora

esto no va a ser la solución definitiva pero es que nosotros no nos planteamos como ustedes el todo o nada es decir

el gobierno español no es equiparable a esto es una reforma que se ha hecho al hilo sucedidos es decir ha hecho falta que desde octubre del dos mil doce la gente

que en esta crisis también la gente se tiraba por las ventanas cuando eso ha obligado a promover

la suspensión por dos años de los desahucios en fin este tipo de cosas pero nosotros ponderábamos y cuantificábamos sobre la directiva porque entendemos que va a dar mucha mayor seguridad va a terminar por lo menos con un montón de prácticas abusivas que nos son infrecuentes y es verdad también se ha dicho se trata de forma muy desigual el sobreendeudamiento de las familias al sobreendeudamiento de los bancos

populista o le parezca populista las directivas o propuestas de directiva que salga de la unión europea yo me he limitado realmente a recitar esas cosas si eso a usted le parece demagogia

de los hechos por lo tanto nosotros traemos esto aquí porque del tenor de esa

en ciernes sin terminar de aprobar pero que alumbrará el ordenamiento de los estados miembros

creemos que supone un gran avance al estado de cosas actual aunque no sea definitivamente la solución ideal a todo luego decía la portavoz de bildu que instamos al gobierno de españa porque es lo más fácil hombre no es lo más fácil es que lo que transponen son los estados miembros cuando euskal herria sea un estado miembro tendrá que transponer también las directivas pero de momento lo hace el estado español o el francés o el lusitano es por esto

hasta donde tengo noticia este parlamento ha instado al gobierno español en varias ocasiones en temas de diferente

y lo que hacemos desde aquí no es otra cosa desde el grupo socialista es

para darle viveza para darle digamos en su alumbramiento ya

si tan semejante es esa reforma hipotecaria que dice la señora llanos que se asemeja a la directiva no tendrá inconveniente es más podría ir haciendo ya como le decían en la primera intervención adoptando algunas de sus disposiciones por lo tanto

al señor maneiro upyd al señor carro partido nacionalista

a esta iniciativa y en todo caso desear que cuando se haga esa transposición que se haga

para eso tendremos una ley de vivienda que alumbrará este parlamento

una solución si no definitiva bastante concluyente nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

beitialarrangoitia con relación a instar al gobierno de españa nosotros no tenemos ninguna pega en instar al gobierno de españa ninguna y además es verdad al gobierno de españa hay que instarle

y claro que estamos orgullosos de lo que está haciendo el gobierno del partido popular

españa está saliendo de la crisis y usted hablaba de cosas concretas pero yo solamente le voy a decir una cosa a una pregunta suya

la tercera y la cuarta la tercera es kutxabank y la cuarta caja laboral me imagino que ustedes no tendrán relaciones

todo tipo de negociaciones a través de las instituciones que gobiernan en gipuzkoa para solventar estos asuntos o habrán roto relaciones con ellos por ser los terceros y los cuartos que más desahucios hacen señor itxaso habla usted de la demagogia de verdad habla de burbuja inmobiliaria de sobretasación del mapa bancario

cuando están detrás de una pancarta es que antes no la ven

ya había problemas pero es que desde mil novecientos setenta y ocho a aquí han gobernado

veintidós años y el ochenta por ciento de los desahucios se han producido en época socialista y usted hablaba de la demagogia de los datos es que desde el año dos mil cuatro hasta el dos mil nueve cuando ustedes se van se pasó

que se dice pronto es que desde la comisión europea

por un cargo nombrado de forma unilateral por el gobierno socialista y no hizo

es que no solamente no legislaban es que tampoco desde las instituciones que podían haber hecho no lo hacía no lo hacían y ahora

de verdad es que lo que dicen en un sitio no lo mantienen en otro mire les voy a decir que

de pago forzosa y el ponente de esta directiva

que es socialista y dice que la dación en pago forzosa agravaría los problemas este señor en europa eso sí ustedes son los primeros que dicen que los escraches a miembros del partido popular para exigir la dación en pago

y usted pone como paradigma la directiva europea pero es que se lo he dicho la directiva europea en muchos casos llega tarde y no aporta nada diferente y no lo dice el partido popular se lo he dicho antes abogados expertos en derecho bancario dicen

la normativa llega tarde y no aporta nada

ya la legislación española y después desmonta punto por punto los siete elementos de la directiva diciendo que muchos de ellos después de esa modificación insuficiente según ustedes

o va más allá de lo que dice la directiva europea es que demagogia de los hechos no demagogia de los hechos no

ustedes se les llena la boca y se les llena la cabeza de ideas

cuando están en la oposición pero es que cuando están en el gobierno no hicieron nada no hicieron nada

muy desafortunada pero es que el gobierno del partido popular desde que llegó empezó

seguro pero lo ha hecho de forma posibilista qué hay que hacer más cambios sí y de hecho ya lleva dos modificaciones en materia de derecho hipotecario ustedes ninguna

con veintidós años en el gobierno y yo

y segundo porque como les decía claro que estamos orgullosos de las reformas que está emprendiendo el gobierno de mariano rajoy porque es la que nos está saliendo de la crisis porque la política de brazos caídos y de no hacer nada que hicieron otros ese nos llevó a donde nos ha llevado

y la tercera estamos de acuerdo pero con la segunda nos abstendríamos porque sinceramente

ya va la legislación más allá si tiene que ir más allá tendrá que ir en otros aspectos que no están contemplados en la directiva europea y en los que seguro que la normativa española será

yo señor itxaso no permitiría que esta iniciativa se votará por puntos pensamos que está bien

como usted lo considere no pensaba intervenir pero he bajado a la tribuna cuando la señora llanos me ha dicho aquello de

no pensaba intervenir pero efectivamente bajo para decirle que lo que el partido popular ha hecho es una cosa bastante parecida a lo que ha hecho el partido socialista y se acerca más bien a la nada que otra cosa se ha hecho muy poco se ha hecho muy poco durante

durante los últimos dos años a nosotros nos parece bien que el grupo socialista haya presentado esta iniciativa sea o no coherente con lo que hicieron cuando estuvo en el gobierno nos parecen bien las propuestas de la directiva europea nos parecen positivas

insuficientes pero en todo caso el asunto es que todo

en el congreso de los diputados y ustedes han sido los que han gobernado no durante los últimos años sino siempre ustedes han gobernado siempre españa y nunca

al parlamento vasco para que nosotros instemos al gobierno de españa cuando ni siquiera tenemos

algún otro grupo por lo tanto llamo la atención en relación a la responsabilidad de los gobiernos nos pueden decir no ustedes no gobiernan cierto

aunque sea en minoría pero ustedes son los que gobiernan y por lo tanto ustedes son los que tienen las responsabilidades de impulsar la modificación de toda esta normativa claramente injusta

porque el asunto de los desahucios no viene de los últimos meses ni mucho menos viene de los últimos años y ustedes estuvieron de brazos cruzados nosotros con un diputado

presentamos iniciativas ciertamente interesantes en relación a todos estos asuntos presentamos iniciativas en relación a la dación en pago presentamos iniciativas en relación a las cláusulas abusivas presentamos iniciativas en relación a los intereses de demora presentamos un proyecto de ley en relación a la dación en pago

oportunidad todo esto fue lo que hicimos en muchos casos estas iniciativas no se aprobaron en otros casos estas iniciativas

de sus grupos políticos pero es que en muchos casos aunque fueron aprobadas el gobierno tanto uno como el otro no las tomaron en consideración

este es el drama que tenemos y yo les pido sinceramente y con toda

que no nos aburran con sus luchas partidarias con los enfrentamientos partidarios del y tú más porque usted no hizo lo que debió hacer y viene ahora

ustedes han sido los que han gobernado ustedes son los que gobiernan ahora impulsen todas las reformas legales que sean necesarias para acabar con

no vienen del cielo vienen de sus políticas de las políticas que ustedes han aplicado durante los últimos años

de ser un solo parlamentario en este parlamento un solo diputado en la primera legislatura en el congreso de los diputados cinco ahora con esa humildad porque efectivamente representamos

y les recuerdo que son ustedes los partidos políticos mayoritarios

el que gobierna ahora no nos aburran con sus luchas partidarias y hagan y no hablen tanto por favor gracias eskerrik asko maneiro jauna

el criterio mío y de mi grupo es coincidente con el de el señor maneiro y sintiéndolo muchos haremos una votación única

el grupo popular presenta una iniciativa para la que desde ahora pedimos el voto favorable porque

una iniciativa que procede de

las asociaciones a las que desde aquí quiero dar la bienvenida porque han querido

queremos agradecerles la iniciativa y reconocerles

en favor del colectivo de personas con discapacidad auditiva personas sordas y personas sordo ciegas las asociaciones están demostrando

de estrecheces y de angosturas presupuestarias y comprendiendo y siendo conscientes de la actual coyuntura están siendo capaces de hacer más con menos este grupo parlamentario confía en que también hoy todos nosotros como representantes públicos estemos a la altura de lo que nos pide la ciudadanía y seamos capaces de dejar planteamientos partidistas

el interés colectivo nuestra intención como grupo político es únicamente ofrecer una respuesta a la demanda de un colectivo que persigue superar barreras

igualdad de oportunidades un colectivo que lo pueden constituir según

aunque también es cierto que sería necesario hacer un censo específico que es especialmente necesario

existe todo un marco normativo y de orientación de políticas generales para la promoción y atención de las personas con discapacidad a nivel internacional la referencia clave es la convención de la onu sobre derechos de las personas con discapacidad vigente en nuestro país

a nivel europeo también hay que destacar la estrategia europea sobre discapacidad dos mil diez dos mil veinte que debe ser la expresión de un compromiso renovado para una europa sin barreras su objetivo general es el de capacitar a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente

en la economía y en la sociedad europea también hay que destacar

que tiene por objeto incluir los fines y objetivos del consejo de europa

de ciudadanía y de participación de pleno derecho de las personas con discapacidad

cuyo artículo nueve establece la obligación de que los poderes públicos debemos remover todos los obstáculos para que la igualdad y los derechos de todos sean iguales y efectivos y dimanando de este mandato constitucional encontramos leyes como la lismi

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de cuyo desarrollo nace la ley veintisiete barra dos mil siete

y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva

todo este marco normativo tiene su origen en la creciente pero todavía quizá insuficiente sensibilidad institucional y ciudadana con las personas con discapacidad así la necesaria defensa de las políticas de igualdad hunde sus raíces en la necesario consideración de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas cuyos iguales

tienen que ser iguales y tienen que estar garantizados también encuentra su razón de ser en la maduración de las formas de plantear la vida en comunidad y los sistemas de gobierno que sin unas condiciones efectivas y reales de igualdad la convivencia se deteriora y la democracia se debilita

constituyen uno de los ejes fundamentales para hacer posible que todas las personas sin exclusión puedan participar de los bienes comunes y de la vida en comunidad

dirigidos a prevenir y eliminar la discriminación garantizar la plena accesibilidad universal llevando a cabo medidas de acción positiva para lograr una efectiva igualdad de oportunidades tenemos que tener convencimiento de que cualquiera avance que consigamos en lograr mejores condicionesde los entornos y mejores competencias de las personas con discapacidad para posibilitar su vida autónoma el ejercicio de su libertad de elección

redundará en mejores condiciones para el conjunto

necesitamos por tanto una sociedad más inclusiva más integrada más sensible y más accesible porque todo ello nos hará crecer y nos permitirá presentarnos como una sociedad mucho más justa reconociendo el camino recorrido hasta ahora y los cambios profundos acaecidos en el modo de conceptualizar la discapacidad seguir profundizando en la visión y actitudes de la sociedad ante ella derivando y fomentando los valores sociales de la igualdad con los apoyos necesarios para conseguir su máximo empoderamiento que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y para que puedan ejercer

dentro de esta transformación conceptual de la discapacidad también se ha modificado la concepción de la sordera y de la forma de las personas sordas sobre sí mismas estas han conseguido superar al menos en gran parte a las representaciones y estereotipos sociales dominantes en la actualidad

social en el que la lengua de signos como máximo exponente de la capacidad creativa de las personas sordas se establece

en aras de su desarrollo como personas autónomas que puedan participar de forma efectiva en la sociedad el autoconcepto de las personas sordas ha estado tradicionalmente

que ha tenido una fuerte influencia social afortunadamente como decía asistimos a un período en el que la conceptualización de la sordera va de dentro hacia fuera

de categorización de la realidad y se redefinen en una identidad propia para posteriormente participar plenamente y aportar riqueza a una sociedad cada vez más compleja a través de prácticas y discursos que van transformando positivamente nuestra realidad social la comunidad sorda término que hace referencia

que comparten esos hechos sociales personas que mantienen un compromiso individual con el grupo y que cooperan en una u otra medida con él para esta comunidad decía la utilización de una misma lengua genera conciencia y unidad de grupo y posibilita la participación y la comunicación con las personas oyentes ayudando

comunicativas la lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas es la lengua que les permite establecer canales de comunicación visuales y espaciales

se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad es el elemento que permite el acceso y la transmisión del conocimiento

es un elemento de vertebración de las relaciones individuales y sociales la lengua de signos es una herramienta fundamental para superar la invisibilidad que todavía hoy padecen

compartirán conmigo señorías que en una sociedad avanzada no puede hablarse de una participación real y efectiva de la ciudadanía sin el acceso a la información y a la comunicación por ello es necesario considerar el uso y el conocimiento de una lengua como un derecho vinculado al libre desarrollo de la personalidad y en definitiva al logro de una vida humana digna

de forma inequívoca a este objetivo en españa hasta el año dos mil siete las lenguas de signos españolas siendo lenguas propias de las personas sordas no tuvieron el reconocimiento ni el desarrollo que les correspondía y todo ello a pesar de que numerosas investigaciones

habían puesto de manifiesto que las lenguas de signos cumplen con todos los requisitos de una lengua natural y poseen unas características gramaticales sintácticas y léxicas propias ese año en el año dos mil siete se aprueba como decía la ley veintisiete

y sordociegas algunos estatutos de autonomía se modifican y la incluyen en su articulado

que avanza más en algunas definiciones pero la aprobación de una ley propia en euskadi permitiría ir

la elaboración de un proyecto de ley sobre la lengua de signos en el país vasco nos colocaría a la vanguardia como decía a la estela de comunidades como andalucía y cataluña que ya la tienen nuestro estatuto igual que la constitución recoge la obligación de los poderes públicos de garantizar

y su participación en la vida social política económica y cultural entendemos que en desarrollo y ejecución de nuestro autogobierno debemos

con el objeto de mejorar y ofrecer una legislación también por qué no decirlo más actualizada

las asociaciones la legislación autonómica debe entenderse como un instrumento legal complementario a la legislación de ámbito nacional y que por tanto complete y complemente los derechos y los servicios que recoge la legislación estatal que impulse el aprendizaje y el conocimiento de la lengua de signos

que avance y profundice en los ámbitos de utilización por último queremos hacer referencia a un asunto de suma importancia y que hemos recogido en la enmienda de transacción que hemos firmado

quiero dar las gracias por su disponibilidad con el objeto de ofrecer mayores dosis de seguridad jurídica y establecer un marco regulador que proporcione mayor estabilidad y asegurar con plenas garantías la labor que vienen desarrollando

solicitamos convenios entre el gobierno vasco y las asociaciones de personas sordas con

y termino como empecé agradeciendo a las asociaciones su labor la necesidad de profundizar en las medidas que nos permitan superar barreras eliminar discriminaciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y creemos sinceramente y esperamos el apoyo de todos los grupos que tener una ley

es consciente de la problemática de comunicación que tienen las personas con discapacidad auditiva para integrarse en el normal funcionamiento

entendemos que la comunicación es primordial en todos los ámbitos de la vida por eso en aquellas instituciones en que tenemos y hemos tenido responsabilidades de gobierno hemos dado pasos concretos siempre de la mano del sector buscando la integración de las personas con discapacidad

ante sus dificultades de comunicación como ya expusimos en la comparecencia de la asociación euskal gorrak ante la comisión de empleo y políticas sociales eusko alderdi jeltzalea partido nacionalista vasco es sensible con la situación de las personas sordas en los principales eventos de nuestro partido contamos con un servicio de intérpretes para que las personas que padecen esta discapacidad

al resto de los presentes quiero recordar que en el año mil novecientos ochenta se constituye el primer gobierno vasco de la democracia

el partido nacionalista vasco ha trabajado para que todas las personas con alguna discapacidad o con alguna minusvalía

en el quehacer diario de la comunidad eusko jaurlaritzako gizarte politikako esparruan

por lo tanto queda claro la postura de euzko abertzaleak

en este caso así como los esfuerzos realizados para dotarlos de normativa adecuada para su mejor integración

a nuestro entender no es necesaria una ley vasca del lenguaje de signos entendemos que las necesidades y pretensiones manifestadas por esta asociación que recordamos no es la única del sector

a nuestro juicio no es el momento ni existe la necesidad de formular una nueva ley con el consiguiente esfuerzo de recursos humanos y temporales que conlleva nos parecía mucho más eficaz solicitar el desarrollo del reglamento de la ley existente para clarificar conceptos y prestaciones en su caso la existencia de una ley de vasca de signos no va a mejorar la situación del colectivo en euskadi está funcionando bien muy bien me atrevería a decir

evidentemente que todo es mejorable y si el sector así lo demanda podríamos hacer un esfuerzo para mejorar el sistema actual

incluso estaría dispuesto a apoyar una nueva ley si se demostrara las lagunas a cubrir por la misma pero mientras tanto

a continuación paso a hacer un poco de historia que viene a corroborar mis palabras

están suficientemente cubiertas y que no es necesario una ley quiero recordar que la federación vasca de asociaciones de personas sordas se fundó

euskal gorrak se crea con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades de las personas sordas de la comunidad autónoma vasca en todos los ámbitos de la vida

una de las herramientas más eficaces que disponen las personas sordas para la eliminación de las barreras de comunicación es el servicio vasco de intérpretes de lengua de signos y guía de intérpretes

el trabajo que realizan estos profesionales permite que las personas con discapacidad auditiva accedan a la información de manera fiable y pueda expresarse y tomar decisiones

el servicio de interpretación de la lengua de signos cubre la mayor parte de los servicios de las personas usuarias solicitan consultas médicas y hospitalarias búsqueda de empleo

asesorías jurídicas tramitación de documentos etcétera desde su creación en el año dos mil dos esta prestación ha cubierto veintidós

también tienen para mejorar su calidad de vida a eutsi que es un servicio de asesoramiento información y formación para lograr el

esta existencia cuenta con el respaldo del gobierno de gasteiz erakunde

honetan dago como ven sus señorías los grupos con discapacidad auditiva cuentan con soportes para garantizarles la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida y la plena participación en la sociedad quiero destacar que la mayoría de estas ayudas son realizadas gracias a la financiación de entidades públicas y privadas

en la comparecencia que tuvo lugar en sede parlamentaria gracias a un convenio que tenemos con el gobierno vasco llevamos a cabo esta serie de servicios

aporta una cantidad y lo mismo la diputación foral de gipuzkoa de igual modo señaló que tienen un convenio con euskal irrati telebista

en el congreso de los diputados se aprobó la ley veintisiete barra dos mil siete por el que se reconoce la lengua de signos y se regula el derecho a su aprendizaje conocimiento y uso se establecen y garantizan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva

como hemos podido destacar las personas con discapacidad auditiva están totalmente apoyadas y respaldadas por las instituciones vascas a pesar de ello el grupo popular

para la elaboración de una ley vasca que regule el uso de la lengua de signos señora llanos ni el grupo euzko abertzaleak nacionalistas vascos ni este gobierno ven necesaria la creación de una ley de signos porque las necesidades de las personas con problemas auditivos

reciben el apoyo el respaldo y la solidaridad de nuestras instituciones

ciudadana de sus miembros creemos que la demanda que solicita el partido popular no conllevaría ningún avance positivo para las mencionadas asociaciones de personascon discapacidad auditiva los grupos parlamentarios popular y socialista han firmado una enmienda transaccional entonces nosotros el grupo euzko abertzaleak

por supuesto donde pide la ley nosotros no estamos por aprobar esta ley porque creemos que no es conveniente entonces votaríamos en contra pero a los otros dos puntos al segundo y al tercero

arratsalde on en primer lugar saludar a las personas que están en este momento en la cámara

y sentir mucho algunas personas que no han podido venir como consecuencia del cambio de punto y de la hora y de cómo está el tiempo que hay muchas personas que también hubieran venido

debatimos hoy sobre la elaboración de una ley que regule el uso de la lengua de signos y voy a empezar diciendo que las personas sordas y sordo ciegas que quieren seguir este debate no podrán hacerlo porque en esta cámara no tenemos servicio de intérpretes de lengua de signos

hoy mismo ha registrado una iniciativa en este sentido que esperamos sea apoyada por todos los grupos porque no podemos instar a otras instituciones

no rompe con la barrera de comunicación que tenemos con las personas sordas

en total suponen un dos por ciento del total de la población de euskadi aproximadamente y casi un tercio de las personas con alguna discapacidad

lo cierto es que ellos son un colectivo importante

con una barrera de comunicación que les impide conocer lo que aquí debatimos y que les afecta tan directamente

en superar en la inserción social de la comunidad sorda

hace unos días escuchamos a la federación vasca de asociaciones de personas sordas euskal gorrak y fue en la creencia de que todas las asociaciones de personas sordas y sordo ciegas del país vasco estaban federadas en euskal gorrak

elaboró su enmienda sin embargo la realidad es muy diferente existen muchas más asociaciones que no están federadas

desde aquí saludo a la asociación para el empoderamiento de las personas sordas de euskadi en los ámbitos

federación vasca de asociaciones de padres y amigos de los sordos fedapas asociación pro personas sordo ciegas de euskadi

eshie asociación de personas sordas de gipuzkoa

el botxo asociación de atención a personas con pérdida de audición zentzumen asociación de implantados cocleares de euskadi aiceus asociación de tinnitus de euskadi atinneus

alguna más el grupo socialista entiende que la elaboración del proyecto de ley que regule el uso de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación

de euskadi debe ser consensuada previamente con todas las asociaciones y organizaciones que trabajan en el ámbito

y debo decirles señorías que este debate ha despertado un gran interés entre todas las asociaciones y organizaciones que trabajan con personas

con algunas de ellas y la semana que viene seguiremos con la ronda el desarrollo de la lengua de signos

en la que se establece la provisión de recursos para facilitar el aprendizaje de la lengua de signos

subtítulos en los medios de comunicación publicidad cine teatros es muy lento porque

están perjudicando de manera notoria a las personas sordas y sordo ciegas en todos los ámbitos y esto es una realidad palpable y evidente que no debemos obviar por ello si esta cámara decide dar a la elaboración de una ley propia para nuestra comunidad será para mejorar la estatal tiene que ser con el convencimiento

la ley tendría que venir acompañada de un proyecto económico que proyecte hacia los próximos años medidas concretas

a que se haga efectivo ese reconocimiento en relación con la enmienda a la totalidad presentada por el grupo nacionalista en su primer punto insta al gobierno vasco a seguir apoyando el servicio de intérpretes de lengua de signos y de guía intérpretes de lenguas de signos

que los servicios más importantes como el de interprete

entre otros tiene que ser eficiente y satisfactorio para las personas usuarias y debe llegar

no solo nos debemos conformar con seguir apoyando el servicio de intérpretes y guías interpretes de lengua de signos además debería existir un control sobre las subvenciones

sea para los fines que fueron concebidas y esto le corresponde a las administraciones públicas

las asociaciones proponen que se apliquen instrumentos para el diagnóstico de necesidades de las personas usuarias y la medición del grado de satisfacción de las personas usuarias con procedimientos directos entre las instituciones públicas y la población en su conjunto muchas de las asociaciones abogan porque las instituciones diputaciones forales y gobierno vasco se hagan cargo de los servicios como una única forma de garantizar los derechos más básicos de las personas sordas y sordo ciegas en relación con el segundo punto donde se insta al gobierno vasco a tratar con las distintas asociaciones dedicadas a la sordera y a la sordo ceguera

antes de tomar ninguna medida al respecto está bien considerar a la sociedad civil pero señora albizua usted solo habla de un servicio de intérpretes

que regule el uso de la lengua de signos que implica muchas cosas más además he de decirle

de los servicios de intérpretes y guías de interpretes de lengua de signos no partimos de cero

de dieciséis de septiembre por el que se declara como acción directa la organización y coordinación

autónoma del país vasco y en este orden de cosas gestiones administrativas jurídicas médicas

situaciones de emergencia deben ser objeto de un proyecto que permita garantizar el acceso de las personas sordas a todos los servicios y sobre todo

en condiciones de igualdad los servicios para asuntos personales o de contenido sensible citas médicas declaraciones en comisaría asuntos jurídicos y notariales

de guardia reuniones vecinales escolares o laborales trámites administrativos gestiones en entidades bancarias y aseguradoras situaciones de emergencia

cuya financiación organización gestión y evaluación deben ser asumidas directamente por la administración pública vasca garantizando cobertura y equidad territorial esos servicios deben de funcionar los trescientos sesenta y cinco días

interrumpido los servicios necesarios para la cobertura de accesibilidad en eventos organizados o servicios prestados por instituciones públicas también se consideran como servicios

así como los servicios ligados al movimiento asociativo para las gestiones y actividades desarrolladas por las asociaciones y federaciones a instancias de la junta directiva trabajadores y comisiones internas o grupos de trabajo en colaboración con otras entidades también se consideran como servicios asociativos de interés general de modo que la administración pública

adecuada al alcance volumen y naturaleza de este tipo de servicios gestionados y debidamente justificados por las entidades sociales en beneficio de la comunidad sorda el grupo socialista esto es lo que quiere reflejar el acuerdo alcanzado vamos a apoyar como no debe ser de otra manera la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo popular y termino mi intervención con un poema sordo abandonemos los extremos derribemos los muros ni orales ni mudos simplemente sordos

solo provocan dolor basta de extremismos basta de fantasmas no más defensores a ultranza de tal o cual método de una vez por todas

la solución aprovechando las bondades de cada lengua el gesto nos dará su expresión visual y la palabra oralizada el sonido

el bilingüismo caerán los muros de la ignorancia el sol brillará para todos iluminando la oscuridad nacerá

una nueva generación hermanada en sus sentimientos con lengua e identidad propia que dirán que son solamente sordos nada más y muchas gracias

votaré a favor de la transaccional que han firmado los grupos y en caso de que no salga adelante

gracias señora presidenta bien señor albizua hay un refrán que además

viene muy a propósito en este caso

porque de verdad le digo usted y yo estuvimos en la misma comisión en la que compareció euskal gorrak y que usted me diga

allí claro que deseaba la existencia y que apoyaba la existencia de una ley de lengua de signos

cosas diferentes y claro si ya oímos cosas diferentes ponernos de acuerdo es complicado

pero es que a euskal gorrak pudimos oírla

en la propia comisión como le digo pero es que existen como se ha dicho aquí otras asociaciones de personas con problemas

que también han dado su opinión sobre la existencia

una ley de lengua de signos y estas asociaciones dicen literalmente respecto al uso de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral nuestra postura

porque son fundamentales para el desarrollo personal y social y luego nos han hecho llegar una serie de postulados y de opiniones de por qué sería importante la existencia de esa ley yo puedo estar de acuerdo con usted señora albizua que es verdad

tanto desde las diputaciones como desde el gobierno vasco se prestan servicios y se colabora con las asociaciones

en lo que yo no estoy de acuerdo es que usted diga porque también lo dijeron la asociación y también otras asociaciones lo dicen es que todos los servicios están garantizados

si eso fuera así además dada esa querencia por el autogobierno y por tener siempre normativa propia en todo ustedes apoyarían

es porque implica una serie de derechos que tiene una serie de consecuencias económicas porque implica garantizar el uso

de aprendizaje y utilización de la lengua de signos en todos los ámbitos

en la formación y en el empleo en el cultural en el deportivo en el de ocio

en la relación con las administraciones públicas en la participación política y como se ha dicho aquí en los medios de comunicación y en la sociedad de información

porque se lo decía en mi primera intervención existen normativas

las modificaciones de su estatuto han establecido la lengua de signos

establece en el estatuto que es la norma de mayor rango autonómico los poderes públicos aragoneses promoverán la enseñanza y el uso de la lengua de signos española en el estatuto

en cataluña que además de ley propia en el artículo cincuenta se establece esto lo que no entiendo

tienen ustedes en muchos casos por qué teniendo la posibilidad de tener una ley de lengua de signos propia no la promueven de verdad

están a favor de la existencia de esta ley porque ya le digo daría muchas mayores garantías de las que existen

en este momento yo no voy

importancia del tema no creo que hay otros otros asuntos que han salido en el debate como el tema de los recortes como el tema de la prestación

con iniciativas que se han presentado aquí y por ello no voy a entrar porque nosotros con esta iniciativa aunque después ha sido completada

que hemos firmado el partido socialista y el partido popular ha sido completada pero fundamentalmente lo que queríamos es tener un marco normativo propio y lo queríamos porque era una demanda de las asociaciones era una demanda de ellas nosotros

esperamos no sabemos exactamente qué va a votar eh bildu esperamos que la normativa salga y en cualquier caso si no fuera así aprobaríamos porque una cosa le digo señora albizua que se me había olvidado usted no propone en su enmienda el desarrollo reglamentario no lo propone

nosotros en cualquier caso seguiremos siempre trabajando porque exista esta ley y en cualquier caso porque los servicios que se prestan a las personas con problemas auditivos sordas y con sordaceguera sean
cada vez mayores y cubran cada vez todas sus necesidades nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

sí eskerrik asko presidente andrea señora sarasua usted ha solicitado la comparecencia de la asociación

sin oír las opiniones y las inquietudes de estos colectivos que hoy estamos del asunto que hoy estamos debatiendo de la creación de una nueva ley no sería mejor escucharles a ellos ver sus inquietudes ver lo que ellos quieren si quieren la creación de una nueva ley o no no le parece a usted que estamos empezando la casa por el tejado señora sarasua me está hablando usted de subvenciones que damos nosotros el gobierno vasco actual que está dando

creo que también el gobierno vasco anterior dio

controlaban ustedes las partidas pues entonces si controlaban no tiene que haber tanto problema señora llanos

cuando ustedes han estado y están gobernando en el estado español y siguen incumpliendo

a que estatutos se esta refiriendo usted solamente a los que se fotografían el veinticinco de octubre

señora llanos como recoge la editorial de las revista de las personas sordas el faro del silencio del pasado mes de junio

años revindicando sus derechos recorriendo despachos y despachos aulas y aulas manifestación tras manifestación a pesar de

se aprueba la ley cinco barra dos mil tres de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad hasta el veintitrés de octubre del dos mil siete no se refrenda en el congreso de los diputados la ley veintisiete barra dos mil siete por la que se reconocen la lengua de signos del estado español y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva

señora llanos me llama la atención que usted venga a esta cámara a exigirnos una ley vasca que regule el uso de la lengua de signos si tantas ventajas tiene

por qué ha tenido que elaborar esa ley otro gobierno y no ha sido el gobierno de aznar si tanto problema tenía hemos tenido que esperar a que venga otro gobierno a elaborar una ley hubieran elaborado ustedes el partido nacionalista vasco

ha estado apoyando a los colectivos de personas con discapacidades en la comunidad autónoma vasca en todas las instituciones que ha gobernado nuestro partido y gobierna en la actualidad ha destinado

de su presupuesto a las políticas sociales en la presentación de este proyecto de presupuestos

aseguraba que el proyecto de presupuestos dos mil trece ascendía a la cantidad de setecientos sesenta y ocho millónes de euros

arrojando una diferencia positiva de ciento cincuenta y cinco millónes

la prioridad de este gobierno es atender los servicios y las políticas sociales tales como sanidad educación o los servicios sociales basta con efectuar un rápido vistazo al proyecto de presupuestos dos mil catorce

a la federación vasca de asociaciones de personas sordas de euskadi y el actual ejecutivo urkullu ha aportado ciento noventa mil trescientos setenta y ocho coma treinta y tres euros a euskal gorrak señora llanos me quiere decir cuántos euros de su presupuesto ha aportado la diputación foral de álava a euskal gorrak

y según nos dijo el señor ortega en la comparecencia había aportado a la diputación foral de bizkaia

a la iniciativa que nos han traído hoy el partido popular este grupo parlamentario no respalda porque no vemos las necesidades que pretende cubrir con la misma el propio colectivo en su conjunto tampoco lo tiene claro la necesidad de una nueva ley lo que reivindican y que nuestro grupo apoya es un servicio de calidad con intérpretes de lengua de signos por último mencionar

nos explicaron una serie de servicios y programas que euskal gorrak quiere poner en marcha

y ya está tomando medidas para poder garantizarles algunos de estos servicios a la asociación euskal gorrak como ven este gobierno

las personas están en primer lugar eskerrik asko eskerrik asko albizua

vamos a ver por dónde empiezo a ver

y las personas tenemos vida pero si quiere yo le cuento dónde estuve ayer

este es la ley que ya han elaborado algunos colectivos por lo tanto

pues mire sí van a venir y a instancias del grupo socialista y sabe por qué porque cuando a mí me tocó hacer la enmienda pensé que las

y estuve trabajando en una federación y allí estaban todas las asociaciones

y entonces claro que hay que hablar con las personas porque las leyes son para las personas no son para una federación o para una asociación no no no no las leyes que se hagan

no están en euskal gorrak que es que parece que ustedes se olvidan de eso me parece muy bien que subvencionen y que convenien programas si eso

lo que hay que hacer es controlar y saber la opinión de las personas que reciben esos programas

ya los oiremos aquí en esta cámara en fin

ustedes no quieren una ley por qué no quieren una ley porque esto es euskadi euskal herria aquí tenemos pues por supuesto todo el derecho a desarrollar una ley

si el que haya una ley estatal no impide que nosotros tengamos nuestra propia lengua de signos

que yo casi hago así con las manos porque ha reconocido que es

aquí aquí tengo yo lo que dice mintzan gor

para el emponderamiento de las personas sordas de euskadi

empiezan diciendo somos una asociación independiente de subvenciones de lo cual se deduce que en la actual debate político las decisiones que tomemos en ningún momento se verán afectadas por intereses económicos

proposición de ley relativa al uso de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas alabamos cualquier esfuerzo público o privado encaminado a mejorar la calidad de vida o calidad del servicio en relación con el colectivo de personas con discapacidad auditiva o sordoceguera y al mismo tiempo nos vemos

y demandas reales de dicho colectivo es una labor compleja que requiere de la participación y del consenso por parte de las entidades representativas de personas

intérpretes y guías intérpretes de lo contrario aunque se emprenda cualquier acción con la mejor de las intenciones siempre habrá personas que a título individual

por otra parte confiamos en que el parlamento vasco sabrá valorar la conveniencia de dar forma y sacar adelante esas nuevas leyes tan necesarias estableciendo en cada fase las fórmulas de participación y órganos consultivos que se consideren oportunos de modo que el término del trabajo realizado podamos afirmar

innumerables barreras de comunicación con la que nos enfrentamos a diario las personas sordas y sordociegas la sociedad vasca no será una verdadera sociedad mientras no podamos disfrutar de una equiparación real en derechos y en oportunidades

y medio de apoyo a la comunicación oral nuestra postura es que se saque

una ley que los reconozca y regule porque son fundamentales para el desarrollo personal y social por tanto estas son las palabras de las personas sordas

así que señora albizua mucho me temo que no coinciden con las suyas eskerrik asko sarasua andrea maneiro jaunak ez du hitzik hartuko